pues una vez más venimos a debatir sobre e i te be y en esta ocasión sobre etb uno y la mala gestión o inacción

e i te be que no es otro que la difusión y el fomento del euskera tal y como recoge la ley cinco barra mil novecientos ochenta y dos de veinte de mayo de creación del ente público

ley por cierto que como todas sabemos se ha quedado obsoleta y que estamos intentando actualizar en el marco de la ponencia no voy a repetirme con lo ya explicado por la señora

referente a la disminución presupuestaria así que voy a omitir esta parte y voy a hablar de otra parte otra realidad

etb uno que treinta y siete años después de la ley tiene que ver también con las audiencias y como ya sabemos

del euskera básicamente porque no llega a nadie y también tiene que ver con un canal que tiene una programación obsoleta que no engancha con las audiencias euskaldunes es verdad que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando pero también es cierto que este problema de audiencias de etb uno

desde elkarrekin podemos hemos defendido siempre la función pública de e i te be y como no podría ser de otra manera la promoción difusión y normalización del euskera

para nosotras son cuestiones que tienen que ver con esa misión de servicio de e i te be diagnosticar

un fracaso empezar a poner soluciones es un primer paso para revertir esta situación

y contenidos propios y esto requiere de una mayor inversión económica como ya hemos hablado además de un clima favorable de unos equipos y de un proyecto que sea ilusionante seguir como estamos sin hacer nada sin un proyecto ilusionante supone asumir que no hay nada que hacer o que intentarlo no merece la pena o ese es el mensaje que nosotras

de la dirección de e i te be y nosotras lo tenemos claro no hacer nada o no intentarlo no es nuestra posición desde elkarrekin podemos estamos convencidas de que etb uno tiene mucho que aportar a favor del euskera y estamos convencidas de que se pueden hacer muchas cosas para que la audiencia vea eitb se trata

quienes estudiamos euskera en fin todas aquellas personas que tienen interés por ver la tele en euskera se sientan interpeladas y encuentren productos audiovisuales atractivos de calidad y variados

que el modelo de eitb está sujeto a la revisión en la ponencia y seguro que hoy vamos a volver a escuchar ese mantra que dice que esto hay que trabajarlo en la ponencia que para eso tenemos la ponencia y bla bla que llevamos mucho tiempo con la ponencia y no terminamos de cerrarla

alcance cuanto antes los acuerdos necesarios para elaborar su dictamen que servirá de base para la reforma de la ley de eitb pero en el mientras tanto

y de la misma manera que hemos aportado iniciativas propias sobre diferentes temas algunos relacionados con el euskera en eitb como por ejemplo realizar un programa de aprendizaje

aquellas iniciativas que vayan en esa dirección que no es otra que etb uno sea una herramienta que sirva de forma eficaz en la transformación del euskera y de la cultura vasca por todo ello vamos a votar a favor de la iniciativa tranzada con el grupo parlamentario de eh bildu que recoge

hoy no vaya a salir adelante porque son propuestas tan simples como solicitar al parlamento que se ratifique en los principios básicos de la ley de creación de eitb es decir

y otro punto que es instar al gobierno a que dote

informativos en euskera a emitir por ambos canales de etb

propia cadena asimismo que ese aumento recursos económicos se refleje entre otros en el contrato de programa en dos mil veinte algo tan sencillo pero que parece que es muy complicado de aprobar por las distintas formaciones políticas sobre todo por el gobierno esperamos escuchar cuáles son sus argumentos para decir que no a esta iniciativa si es que realmente le va a decir que no que parece que

me gustaría escuchar los argumentos para decir que no a esto eskerrik asko eskerrik asko arana

gracias señora presidenta buenas tardes a todas bien

la cuestión de la ponencia y de la reforma porque además tiene mucho que ver yo creo que en esa ponencia lo que los grupos estamos intentando

en las conclusiones es en la filosofía que debe tener eitb

de eitb las finalidades que existían en el momento de la creación del ente y que yo creo

en otras ocasiones considero totalmente procedente y posible que al margen de que tengamos la ponencia hay cuestiones que se pueden perfectamente debatir

porque son importantes y porque dado que está tardando

soslayar nosotros estamos de acuerdo

fundamentalmente de acuerdo con lo que pone de manifiesto en la iniciativa en su justificación porque además lo hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones en esta cámara la difusión del euskera y de nuestra cultura propia debe ser una esencia de eitb y no solamente porque lo ponga la ley de creación del ente sino porque forma parte de la propia filosofía del ente

propia es fundamental y es más no solo aparece en la ley de creación del ente ese papel

sino que también aparece en el contrato programa y aparece también en el plan estratégico de eitb como servicio público que son nuestra radio y nuestra televisión pública deben de cumplir esa misión de impulsar el uso del euskera

el contrato programa lo que viene a definir es los contenidos de la misión de servicio público que tiene asignada eitb

de ese servicio público los compromisos que asume para su prestación las actividades y los objetivos

del gobierno vasco en relación a la financiación del ente por ello como digo la promoción del euskera y en una sociedad cada vez más bilingüe

debe promover la difusión de contenidos creaciones actividades elaboradas y desarrolladas en euskera en los distintos ámbitos sociales y reflejar esas emisiones de la realidad social bilingüe y fomentar la puesta en valor del bilingüismo como elemento

también como decía antes el plan estratégico establece como una de sus líneas concretamente en la línea tres lo dije a propósito de otra iniciativa que

con relación al euskera y eitb pues ese punto tres precisamente se refiere también a esa promoción en eitb del euskera luego yo creo que el papel que eitb debe tener en la enseñanza en el conocimiento y en la difusión del euskera está claro aparece recogido en la ley de creación del ente en el plan estratégico y de lo que se trata es de llevar a cabo acciones precisamente que hagan efectivo ese

la importancia que tiene como misión para difundir el euskera de entender en euskera de informar en euskera de entretener

y uno y lo compartimos también con la iniciativa uno de los instrumentos claves para que

pues como medios de entretenimiento de ficción de producción

la proponente ya sea doblada o sea subtitulada y compartimos con la proponente

está quedando absolutamente desfasada en la difusión del euskera pero lo ha dicho la propia proponente la cuestión cuál es es el presupuesto

o es la filosofía que se está aplicando en este momento porque eitb es verdad debiera de ser etb uno debiera de ser el buque insignia del ente

la razón de su existencia fundamentalmente de nuestra televisión pública debiera de ser etb uno

es la hermana pobre en la ficción es la hermana pobre en los informativos es la hermana pobre en todo

siendo la única televisión euskaldun en euskadi en septiembre

no llegaba al ocho por ciento en su audiencia siete coma nueve

entonces a veces cuando se le pregunta a la dirección por cómo cumple esta misión pues simplemente lo que nos viene a decir es cuál es el número de horas que se emite en euskera como si eso ya fuera el único ratio y la única cuestión que nos pudiera medir si se cumple con ese objetivo o no pero yo creo que y lo hemos dicho en muchas ocasiones no solamente este grupo sino creo que también otros el número de horas no refleja si se cumple la misión o no se deberían de tener en cuenta otros valores para ver si se cumple ese objetivo o no y si se utilizan otros criterios ver qué tipo de programas se emiten la calidad se esos programas si esos programas al final consiguen enganchar con la audiencia

y es verdad que las audiencias no pueden ser el único indicador a tener en cuenta pero también es uno de los indicadores que nos

cuál es el enganche que los ciudadanos y las ciudadanas vascas tienen con eitb

atractivo y fundamentalmente y en lo que nos ocupa ahora pues si puede cumplir o no ese objetivo de la difusión y de la promoción en euskera porque no nos olvidemos estamos en un momento en el que la sociedad es cada vez más euskaldun y sin embargo el interés

es cada vez menor con lo cual yo creo que eso debiera de hacernos pensar a todos y lo que no nos vale a este grupo por lo menos es decir que es que los jóvenes

tienen otra forma de ver televisión de acceder a los medios de comunicación sino que lo que yo creo es cuestión de plantearse que a lo mejor el problema es que hay que ofrecer bueno pues programas más atractivos y que puedan atraer al público

si admiten la votación por puntos de la enmienda de transacción nosotros votaríamos a favor del primer punto y en contra del segundo y por qué se lo voy a explicar porque nos proponen un aumento del presupuesto de

que ella entendía perfectamente que la dirección de eitb

porque lleva dos legislaturas en el cargo lleva dos legislaturas y vamos visos de corrección no apunta no e inicialmente

por qué porque la directora de eitb achaca el fracaso de las audiencias tanto en castellano como en euskera a la disminución del presupuesto nos dijo además nos hizo una comparativa de los presupuestos que había hace unos años y de los que hay ahora

a cualquier cosa a cualquier cuestión que nada tenga que ver con la gestión que ella y su equipo está realizando es verdad que lo que

no es algo consustancial ni al partido nacionalista vasco

pero la cuestión que acaba de preguntarse es de verdad todo se arregla con el presupuesto con un aumento de presupuesto por poner

y vamos a ver si es realmente escaso porque supone sesenta y tres coma diez euros por habitante y vamos a ver otras televisiones autonómicas

dieciséis coma cinco euros por habitante vamos a ver otras por ejemplo con idioma propio la de galicia tiene

la de cataluña a pesar de la inyección que el señor torra le ha proporcionado este año que ha sido

cuarenta y tres euros por habitante bastante superior a la que tiene e i te be que como digo son sesenta y tres euros por habitante

otras de este mismo del presupuesto del gobierno vasco pues vemos que e i te be tiene un presupuesto que supone la mitad de las prestaciones de asistencia social nos gastamos trescientos veintiocho millónes de euros en rgi y prestación complementaria de vivienda y ciento treinta y siete millónes en eitb pero es que nos gastamos prácticamente lo mismo

y hablamos de audiencias para comparar presupuestos y audiencias pues en mayo de este año según estudio de barlovento tenemos que la que lidera la audiencia dentro de las televisiones autonómicas es te uve tres que ronda el trece por ciento y la de galicia más del diez por ciento y ya hemos visto nuestra televisión ya lo he dicho antes

porque ahora aquí se pide que se aumente el presupuesto también como digo la directora dijo que el problema

cómo va a recaer en ella pero la cuestión que acaba de preguntarse es el problema no será un problema de la dirección no será un problema de la gestión de su equipo como decía ya sé que no es muy de este gobierno

pero debiera de planteárselo porque las audiencias no repuntan porque vemos

que en audiencia son los últimos los últimos los últimos

no hablan de la corrupción aquí no hablan de los problemas de aquí no hablan de lo mismo que el resto que susana griso el mismo que la uno el mismo de no sé qué no hablan de lo mismo

de los problemas del gobierno de españa claro hablar del gobierno vasco de sus problemas de si aumenta el paro en euskadi no de eso no hablan de eso no hablan claro como hablan de lo mismo que el resto de las televisiones pues los vascos ven el resto de las televisiones

yo creo que el problema no es un problema de dinero es un problema de gestión es un problema de redistribución del presupuesto y de que realmente se gaste y como me ha faltado ahora tiempo lo diré después que se gaste donde se tiene

como digo estoy de acuerdo con el primer punto y votaremos en contra del segundo eskerrik asko

bueno pues muchas gracias presidenta buenas tardes consejero

señora arana señora llanos yo creo que vamos a empezar por lo que nos une y es que coincidimos en parte

y nosotros en el nuestro como todo el mundo sabe desde el grupo socialista llevamos muchos años defendiendo un impulso a la producción de euskera en etb que se canaliza efectivamente y básicamente a través de su primer canal hemos repetido también que decía la señora llanos el mismo término que este debiera ser el buque insignia y el elemento diferenciador

a cualquier otra oferta televisiva que las vascas y los vascos podamos recibir en nuestros hogares o en nuestros teléfonos móviles o en nuestros ordenadores porque contamos en realidad con muchas posibilidades en castellano pero de forma pública solo

y seguimos manteniendo esa apuesta y la mantenemos siempre de una posición firme de que esa producción en nuestra lengua propia puede y debe aumentar

pueden y deben seguir desarrollándose para que los productos de calidad en euskera puedan también ser seguidos por quienes desconocen este idioma nuestro idioma a través

y también como hemos señalado en múltiples ocasiones constatamos que ha habido un incremento de este tipo de producciones con criterios de calidad audiovisual pero que etb uno sigue contando con una gran carencia que es el referente informativo para esa mitad en la población de euskadi que dice conocer el euskera y es un déficit que se arrastra porque cada vez que hay un hecho relevante

la apuesta informativa de etb sigue volcándose en su canal en castellano lo hemos acabado de constatar con todo lo que ha venido ocurriendo en cataluña en los últimos días programaciones especiales a tutiplén

y no en el primer canal cuando ya hay otro mogollón de ofertas televisivas otras televisiones que están ofreciendo información en castellano una información al minuto pero esto

transaccionado con elkarrekin podemos una proposición que por cierto es una enmienda presupuestaria y he de recordarles que el momento de la discusión del debate presupuestario todavía no ha llegado pero

discrepamos también de lo que se pretende y es efectivamente señora arana poner en valor la ponencia que el debate sobre los canales del futuro servicio audiovisual público vasco estamos todavía dibujándolo en la correspondiente ponencia parlamentaria que para eso están los trabajos

tiempo trabajo y que estamos esperando que se cierren

ya lo dijimos en una comisión en una reunión de la ponencia no hace mucho que podemos hacerlo

en la comisión hace apenas diez días en una comparecencia efectivamente en que la directora general también apuntaba las dificultades para lograr una mayor fuerza del euskera y allí se habló de esa paradoja en la que coincidimos todos y que nosotros también señalábamos de que por qué

el euskera la audiencia sea más baja y de la paradoja de que una televisión que empezó casi íntegramente en euskera

hasta que el canal en castellano se impuso con claridad entre las preferencias de la ciudadanía vasca hay muchos factores históricos y no voy a recordar ahora por qué nace etb en el año ochenta y seis el contexto político en vísperas de unas

tampoco hablaré de las dificultades históricas para conectar con los euskaldun zaharraz

eso saben ustedes porque se lo he enseñado yo lo tenemos bastante analizado los socialistas nosotros tenemos

respecto a la financiación y lo presupuestario lo que nosotros defendemos es que haya un contrato programa donde se fijen objetivos que sean evaluables y que reciban su financiación en función de la consecución de estos dichos objetivos

hoy aquí el debate que se nos propone hoy aquí compartiendo porque creo que compartimos todos

que aumenten los recursos para producir en euskera el método no es el oportuno con la actual formulación presupuestaria

y con la correspondiente intervención parlamentaria es cambiar la forma de hacer ese contrato programa que a día de hoy lo suscribe el propio gobierno

quien propone quien dirija el ente lo que nosotros

el que deba aprobar el gasto de todos sus servicios públicos y el que defina lo que espera del servicio audiovisual y también a la producción en euskera y que por tanto ese contrato programa sea aprobado por esta cámara y por lo tanto modulado en su caso a lo largo de los años de ejecución también por esta cámara

que forma parte de nuestros debates en el seno de la ponencia para la reforma integral de etb cómo financiar los debe ser la hora

los objetivos que pretendemos lograr y tengan todos la seguridad

que creemos que además es posible no se ría señora arana porque me está poniendo usted en una situación un poco complicada

en cualquier caso eh agirre perdón

parecido no me refiero no me refiero a los apellidos bueno en cualquier caso lo que quiero

pero lo que nos sorprende es que estando tan cerca insisto la posibilidad de llegar a un

haya propuestas que como esta no permiten hacer un cambio en el modelo que queremos tener lo que vamos a hacer es consensuarlo y lo podemos consensuar en la ponencia este es un debate presupuestario y en este

el modelo que pretendemos consensuar nos va a permitir funcionar de una manera muy distinta por eso compartiendo la necesidad de que

no entendemos que la oportunidad de este debate que nos acaban de traer hoy no voy a entrar

turno en relación al importe del incremento presupuestario que se

porque de hecho la iniciativa original habla de un diez por ciento la iniciativa la enmienda de totalidad de elkarrekin podemos habla de un veinte la directora habla de un veinticinco por qué no un quince por ciento y ni pa ti ni pa mí por qué no

pero lo que sí le décimos es que si el grupo proponente o los

esta enmienda en relación con esta pnl

la votación por puntos votaremos a favor del punto primero y en contra del segundo punto gracias eskerrik asko

eskerrik asko lortu dugun erdibideko horrengatik señora llanos lo nuestro es una tragedia

de doce minutos de su intervención creo que estamos de acuerdo en once

en el programa de etb en una cosa no estoy de acuerdo la gestión de eitb puede ser mala pero el diagnóstico lamentablemente me parece que es bueno y ese el problema que el diagnóstico de la dirección de eitb creo que es bastante

solo tienen trabajan en un solo idioma y etb trabaja en dos idiomas por lo tanto no se puede comparar la señora

pero el pedir un aumento de presupuesto ya en sí es un cambio de filosofía que es lo que hace falta

en euskera frente al canal de castellano arrizabalaga andrea

agirre anderea elkarrekin podemos arana

hablar desde el escaño lo hago desde aquí señora llanos

lo sabe y sabe que sabemos el resto pero no me negará que ayuda que ayuda a conseguir

probablemente la mala gestión las malas audiencias y que mejoremos bastante lo que hay por ahora

que no se vaya a dar el cierre de la ponencia somos las que más hemos insistido en que los ritmos de los trabajos de la ponencia fueran ágiles

estamos dispuestas a hablar a trabajar para tener un dictamen cuanto antes

hay que hacer cosas y no podemos quedarnos quietas porque cosas se pueden hacer y muchas

voy a entrar en lo concreto porque hay cosas que es mejor no entrar y ya sabe usted a lo que me refiero

decía que en dos mil diecinueve se había comprometido eitb

se había comprometido a cumplir la ley que lleva mucho tiempo mucho tiempo sin cumplirla

no la hemos puesto nunca lo hemos dicho siempre que nos saca el tema cuando planteamos iniciativas una cosa es la gestión y otra cosa el trabajo de los profesionales y en cuanto a la gestión tenemos y creemos que hay muchísimas deficiencias en cuanto al trabajo de los profesionales no tenemos ningún pero y que

uno sea la que es exclusivamente responsabilidad de la dirección a unas causas que hay que analizar y tratar de subvertir besterik ez

gracias de nuevo señora presidenta con relación al tema de la ponencia como ya sabía que iba a salir he hecho en mi primera intervención creo que es perfectamente

al final dar debates por que exista una ponencia

no me parece adecuado y desde luego la iniciativa me parece oportuna me parece oportuno el planteamiento

porque generalmente en los temas eitb solemos estar bastante de acuerdo pero tengo que hacerles una crítica con relación a esta iniciativa es que creo que le están haciendo el caldo gordo a la dirección

porque creo que le están dando la razón en esa exigencia sí señora arrizabalaga porque la exigencia venia de la dirección de eitb de que es un problema de presupuesto es que tengo poco dinero esto como lo que se habla en derecho de los malos pagadores

lo mismo es que tengo poco dinero es que no es cuestión de dinero es que el problema no es un problema de presupuesto lo vuelvo a decir

me comparaba con el recto de las televisiones pues a lo mejor es que hay que redefinir a lo mejor es que etb

qué pasa que no quieren que sea solo en euskera por qué porque hay que hacer propaganda y la propaganda hay que hacerla en euskera y en castellano no vaya a ser que los

entonces claro la propaganda hay que hacerla en euskera y en castellano pero a lo mejor es eso a lo mejor es que nuestra televisión tendría que ser solo una televisión en euskera para cumplir ese objetivo que solamente puede hacer un servicio público como es la etb

y usted hablaba de diagnóstico yo es que estoy de acuerdo con el diagnóstico

exclusivamente en el idioma de la comunidad en catalán y en gallego catorce casi diez casi respectivamente nosotros no llegamos al dos no llegamos al dos en la televisión de nuestro idioma y lo que más audiencia tiene es el deporte y la misa es que lo he dicho muchas veces es que es para hacérselo mirar y aquí lo dije la otra vez

hay un parlamentario que hoy se sienta en esta cámara que a propósito del gobierno anterior hablaban

y como una de las perlas que soltaba su problema es que el centro de producción de programas de miramon esta vacío de contenidos eso lo decía en el dos mil diez

y no llevan un año como llevaban cuando hicieron esas declaraciones partido nacionalista vasco

el problema no será un problema de gestión no será un problema de la dirección de eitb de cómo se está gestionando eitb yo comprendo que la autocrítica es difícil

al lado de autocomplacencia como sinónimo

pnv porque yo con todas las direcciones que me toca o con todas las consejerías que me toca es exactamente igual o sea la autocomplacencia es la nota habitual

es un problema de presupuesto si no se conseguiría más

a productoras amigas siempre a las mismas y algunas íntimamente ligadas con quien se encarga en este momento de la contratación y voy a decir nombre y apellidos como es baleuko

sin concurso alguno y mediante adjudicación directa si no se conseguiría más audiencia invirtiendo en otras cuestiones si no se siguiese adjudicando y encargando programas a los mismos cuyos programas tienen que ser retirados por falta de audiencia e inmediatamente se le concede otro como digo de manera directa si se confiase más en la producción y elaboración de programas por los profesionales de las casas que los hay muchos y muy buenos como decía si el centro de producciones de miramon no estuviese vacío que si estaba vacío en el dos mil diez ahora está ya

si parte de ese dinero se destinase por ejemplo al doblaje como el otro día tuvimos ocasión de ver aquí porque también se hablaba de que la producción propia es importante pero no pretenderemos con el presupuesto

una película como titanic verdad será mucho más sencillo titanic y que los euskaldunes puedan ver titanic en euskera digo yo vamos si parte de ese dinero como digo se emplease en la subtitulación porque ese problema en los tiempos de bonanza económica de los que nos habla la directora que siempre dice que en tiempo pasado había mucho más dinero en presupuesto de e i te be ya existían los problemas de doblaje porque ya nos dijeron el otro día que llevan veinte años con estos problemas

que no todo se arregla con un aumento de presupuesto que pasa por cambiar la gestión

la filosofía del medio público por una redefinición para dar cumplimiento a los contenidos recogidos en la ley de creación del ente

una e i te be que sea un instrumento al servicio de la sociedad vasca de la promoción de nuestra cultura del euskera de ser una televisión que muestre una realidad más cercana pasa porque

de propaganda al servicio del gobierno y de una ideología identitaria pasa por el cumplimiento para el que se creó e i te be pasa como decía por una redistribución del presupuesto para darlo a lo que de verdad importa promocionar el euskera nuestra cultura nuestra realidad y no al gobierno a la realidad
identitaria y al partido que sustenta al gobierno muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

presidenta si se me permite desde el escaño con su permiso y con el permiso de la señora

yo lo único que quería comentar era dos cuestiones

eso puede ser verdad pero normalmente no lo es de hecho la cuestión no es si aumentamos

del que podemos disponer y lo que podemos gastar para seguir haciendo lo mismo se trata de no hacer lo mismo es más incluso podemos hacer cosas mucho mejores

antes en relación con otras televisiones autonómicas vemos que la inversión per cápita

simplemente a tener en cuenta y efectivamente yo coincido con la señora llanos de lo que se trata es fundamentalmente de ese cambio de modelo de un cambio de gestión

objetivos de invertir en programas de actualidad de producción propia

necesitamos igual más dinero pero posiblemente lo que necesitamos fundamentalmente es un cambio de modelo un análisis de lo que tenemos para ir a donde queremos y de lo que se trata es fundamentalmente de definir eso

yo estoy segura que en un breve plazo de tiempo yo creo que además lo comentamos en una de las reuniones creo que estamos

a un documento en el que podamos hacer aportaciones y que en definitiva dentro de nada a la mayor brevedad posible a ser posible a finales de este

un documento medianamente consensuado que nos permita avanzar a una televisión que efectivamente una televisión vasca a un canal en euskera que fomente el euskera que fomente la cultura vasca y que satisfaga todos los principios

que está muy bien porque son los que inspiran en realidad

y que queremos gracias eskerrik asko gallástegui anderea

beti behin eta berriro eta defendatu komeni denean no será que quienes no hacen atractivo etb para los y las euskaldunes son los grupos parlamentarios y no los contenidos pregunto

muchas gracias presidenta lehendakari consejera consejero buenas tardes seré breve que ya las horas avanzan y

yo creo que podemos ser breves es un tema que tratamos el otro día en una interpelación para nosotros era una interpelación de por qué
el incumplimiento isiltasuna mesedez el incumplimiento en relación

prórroga de unas determinadas partidas en el departamento de cultura y deportes y ese era el tema de la interpelación lógicamente la interpelación nosotros no nos sentimos satisfechos de la respuesta y por eso hemos traído esta moción al pleno bueno pues probablemente no salga adelante pero sí que queremos

lo que dice la ley y lo que nosotros acordamos y a los acuerdos que llegamos nosotros

hubiese sido una solicitud de información una pregunta escrita hubiese estado bien se había cumplido la ley dos barra dos mil diecinueve en su totalidad o no con los problemas que podía haber habido

no ha sido así no ha sido así el asunto y desde luego esa solicitud de información

en relación con las cuestiones que planteamos el otro día

dos barra dos mil diecinueve de catorce de febrero de este año de medidas

materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga en el apartado

durante el ejercicio dos mil diecinueve se ajustará al régimen establecido en el título noveno del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de euskadi

se entenderán prorrogadas las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones que figuren nominativamente asignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciocho siempre y cuando no financie programas o actuaciones

finalizar en dicho ejercicio está clarísimo señorías

en respuesta a una solicitud de información sobre prórroga de autorizaciones de gasto a los que se refería el apartado dos de la disposición adicional segunda

efectivamente a esas subvenciones nominativas del presupuesto dos mil dieciocho

pero las subvenciones nominativas del presupuesto dos mil dieciocho que figuraban

en el presupuesto prorrogado e importe total y sobre las que se tiene que

que parece muy sencillo pero parece que para el gobierno no lo es porque estamos viendo que no se van cumpliendo y lo estamos certificando y constatando y estamos en octubre finalizando octubre cercano al fin de año y desde luego el otro día nos quedamos preocupados

que votará en contra de esta iniciativa pero por favor yo le pido sobre todo a los

qué les ha dicho el señor azpiazu en relación con el acuerdo al que llegamos con él para la aprobación de la ley dos barra dos mil diecinueve

no había hablado con el señor azpiazu y tenía él su interpretación de la prórroga decía que no conocía muy bien que era nuevo pero que tenía su interpretación de la prórroga pero por favor

azpiazu pues que nos diga cuál es la interpretación de la prórroga y sobre todo del acuerdo alcanzado para la aprobación de la ley con el señor azpiazu que nos lo

y de los acuerdos a los que se llegan es decir este gobierno no cumple sus acuerdos o qué

en relación con la reforma fiscal a la que se había comprometido en relación con algunas cuestiones que habíamos hablado y habíamos acordado no cumple sus acuerdos

a familias con hijas e hijos en conciliación familiar partidas como las que estamos hablando no es decir y porque

pues en este caso en este caso que estamos hablando una cosa muy concreta

y acordado y por eso aprobamos y votamos la ley dos barra dos mil diecinueve el señor consejero

en la interpelación no entendía no sabía

no sabía interpretaba la prórroga a su manera pero

espero que el portavoz del partido nacionalista vasco fundamentalmente me pueda decir

a cumplir con esas partidas además el otro día en la interpelación el señor

nos dijo que él ya había encontrado la fórmula para la prórroga

azpiazu pero él sabía la fórmula de la prórroga y dijo que coge el dinero de las partidas

del dos mil dieciocho esas que habían venido en la información documentada

el dinero de las partidas prorrogadas y las utiliza para lo que él quiera cuidado para lo que él quiera porque tiene una autorización de gasto tiene una autorización de gasto

para lo que yo quiero no pues eso en materia presupuestaria

es que hace saltar todas las leyes presupuestarias y administrativas en relación con el gasto público es decir

todo eso está atado y por eso nosotros hemos presentado esta moción porque

que tiene autorización para el gasto de esas partidas para lo que le dé la gana no

y las normas presupuestarias son rígidas son estrictas se podrán cumplir o no cumplir se podrá llevar a efecto el cumplimiento de la partida o no por determinadas cuestiones pero

es decir es que esa interpretación suya hacía saltar por los aires cualquier rigor presupuestario cualquier rigor administrativo

o que probablemente sobre todo los grupos de la oposición pues no les importe mucho no se sienten concernidos

del grado de cumplimiento de algunos acuerdos con los que se llegaba con el gobierno vasco que hay acuerdos que se llegan y que luego

con ese grado de cumplimiento por tercera vez se llegó a un acuerdo con el gobierno con el señor azpiazu

y para la aprobación de la ley dos barra dos mil diecinueve

tampoco estaba el otro día pero en cualquier caso alguien habrá hablado con él y nosotros en ese sentido y después de la sustanciación de la interpelación pues hemos presentado una moción y la moción es la siguiente

al departamento de cultura y política lingüística del gobierno vasco y por extensión al resto de departamentos del gobierno y de entidades y organismos de ellos dependientes a que el cumplimiento de lo pactada con el señor azpiazu

y estricta de la ley dos barra dos mil diecinueve de catorce de febrero de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio de dos mil diecinueve en materia de retribuciones

hablando y otros aspectos relativos a la prórroga donde estaba esa cuestión proceda

presupuestarias que contienen autorizaciones de gastos con destino a subvenciones nominativamente asignadas

del parlamento vasco y que resultan ser más concretamente las relacionadas en la respuesta escrita remitida

a la solicitud de información parlamentaria tengo que decirles que formaba parte las partidas de la negociación presupuestaria

cultura en materia de deportes pequeñas partidas la mayoría o medianas que afectaban a clubes deportivos a entidades culturales

que bueno estaban esperando y que están esperando esa prórroga porque tenía defectos que ellos entendían

pues bueno yo les pido a ustedes que aprueben la moción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketarik

yo le diría al señor barrio de entrada que quizá se equivocó usted en la formulación primero de la interpelación

usted la dirigió al consejero de cultura y política lingüística y por lo que aquí nos ha venido a decir prácticamente en los cuatro minutos o cinco de su intervención es que

por qué no hizo usted entonces la interpelación el pasado viernes en pleno de control al señor azpiazu igual nos hubiesemos enterado todos y hubiese sido el tema de plena conocimiento y público conocimiento de si realmente habían ustedes acordado o no

dos barra dos mil diecinueve en aquel acuerdo porque lo que usted viene a dejar de manera muy sibilina encima de la mesa

de atrás y ahora quiere exponernos a todos públicamente una especie de desencuentro o de falta de acuerdo

esa prórroga y ejecución de las subvenciones nominativas y algo no concuerda señor barrio y usted

bastante torticera una moción que en lugar de pretender lo que usted nos venía en el sentido literal a plantear en la moción que es que todos los departamentos del gobierno y entidades y organismos de ellos dependientes

presupuestarias en materia de retribuciones se ejecuten y se abonen en definitiva las subvenciones nominativas prorrogadas que vienen de los presupuestos dos mil dieciocho

es que lo que quiere es el cumplimiento del acuerdo con el señor azpiazu cumplimiento de un acuerdo acuerdo que nadie

pues sale usted y se lo comento pero creo que la moción

la intervención que ha hecho el señor barrio como digo la moción en lugar de ser la que viene literalmente expresada en la formulación por escrito por lo que nos ha dicho tiene que ser

y nosotros desconocemos ese acuerdo señor barrio nosotros desconocemos

y como digo estamos hablando de un tercero al cual usted no interpeló y ha desenfocado desenfocó la interpelación y ha desenfocado la moción

usted sabe que la disposición adicional segunda de la ley de medidas urgentes se ha cumplido el señor consejero

las subvenciones nominativas que en su departamento de cultura y política lingüística se habían prorrogado estaban en la prórroga como autorizaciones

todas y cada una de las subvenciones nominativas que han sido prorrogadas y todas y cada una de las subvenciones que han sido trasladadas

finalizaba en el propio año dos mil dieciocho o bien porque incluso

cuáles son esas subvenciones que no se prorrogaban en el capítulo

lingüística y usted tiene esa información por escrito no me estoy inventando absolutamente nada y usted sabe y nosotros también compartimos con el consejero en la respuesta que le dio en aquel pleno de control que esas autorizaciones de gasto hasta que no tienen

se inicia un procedimiento administrativo para su ejecución no producen una obligación de tipo

un derecho a ser adquiridos tan solo constan como partidas presupuestarias

se ha venido estableciendo para todos los departamentos del gobierno que eso supondrá a la larga que si hay determinadas subvenciones nominativas que provienen

con el grupo populares vascos pero que esas subvenciones nominativas

han sido prorrogadas por el hecho cierto de que no ha habido ningún acuerdo presupuestario para el año dos mil diecinueve y por lo tanto se produjo la prórroga automática y tres leyes de medidas urgentes en el mes de febrero para complementar esa prórroga presupuestaria ustedes saben que algunas de esas subvenciones nominativas porque así se lo comentó también el consejero van contra o no responden a los objetivos y a la orientación que deben de tener

de subvenciones nominativas con las políticas que tiene establecidas el departamento tan simple y llanamente como eso por lo tanto si hay subvenciones que provienen de un acuerdo pero que llegan por medio de un desacuerdo presupuestario y que además van o son contrarias

del propio departamento de cultura y política lingüística pues no se ejecutarán aunque estén en las autorizaciones de gasto

tan simple y llanamente como eso pero como vuelvo a decir creo que usted aquí por lo menos ha sido sincero usted lo que quería tratar era el acuerdo del señor azpiazu pues yo lo que le conmino es a que realmente haga usted otra interpelación

de a quién quiere poner en el brete de si hubo o no hubo acuerdo pues sea a otro consejero y no en este caso al departamento de cultura y política lingüística

no solamente al departamento de cultura y política lingüística lo ha hecho

oiga no solamente al departamento de cultura y política lingüística sino a todo el resto del gobierno

socialistas o al menos liderados por responsables socialistas le puedo decir que a ellos desde luego no les llegaron ningún tipo de acuerdo del que usted está haciendo mención

a ese acuerdo o no acuerdo o no ejecución de un acuerdo que se hizo en la trastienda

en evidencia o en lo público en el ámbito de lo público pregúnteselo con quien realmente llegó al acuerdo si es que llegó a ese acuerdo gracias eskerrik asko corcuera

para terminar hoy el pleno nos toca debatir en torno a una iniciativa presentada por el grupo popular

pendientes de ejecución en materia de deportes y de promoción de la cultura y de patrimonio

y esto viene de lejos porque el señor barrio lleva desde septiembre haciéndonos partícipes de esta inquietud suya porque se ejecuten unas partidas presupuestarias que son en su mayoría subvenciones nominativas que se incluían en el acuerdo firmado

de dos mil dieciocho el gobierno le contestó y usted señor barrio decidió seguir preguntando porque no le gustó lo que le respondían pero esta vez en formato de interpelación al consejero

del once de octubre donde usted pide que se cumpla la ley en este caso las leyes de acompañamiento presupuestario y he comprobado cómo el gobierno le contesta casi lo mismo que por escrito

y tuvieron la amabilidad de compartirlo con todas nosotras y así rellenaron ustedes más de veinte minutos de un pleno de control

de esta moción alta política señor barrio eso es alta política

nos parece razonable que se cumplan todas las leyes pero usted sabe que eso no pasa y que no es la primera vez que

y en lo que se refiere al departamento de cultura al que hace referencia la moción que usted ha presentado señor barrio tampoco encontramos más objeto de reflexión

a los presupuestos y al margen de compartir algunas de las prioridades no compartimos las políticas de subvenciones nominativas porque es verdad para nosotras es verdad que es un modelo que no nos gusta y que es muy mejorable entendemos además que aquellas entidades que las perciben necesitan de ese dinero para el desarrollo de sus actividades entendemos que además es un sector maltrecho en un sector maltrecho como es el cultural

o que llegue a tiempo puede ser síntoma o puede ser una catástrofe para ellas pero

no nos gustan porque discriminan porque se conceden a dedo porque no son el método para definir las inversiones públicas y porque fomentan el clientelismo y a nosotras lo hemos dicho muchas veces

a las que cualquiera puede acudir en igualdad de condiciones y donde lo que se hace es valorar el proyecto así que francamente se nos hace bastante complicado encontrar motivo alguno para oponernos a que la ley se cumpla de la misma manera que se nos hace difícil de entender

que pide que se cumpla la ley y se abonen las subvenciones nominativas mencionadas señor barrio por lo tanto nos vamos a abstener y rogamos que usted en futuras intervenciones

en el ámbito de la cultura y en el ámbito del deporte más allá
del mantra de qué hay de lo mío eskerrik asko eskerrik asko garcía

a la jurídica no le voy a dedicar demasiados esfuerzos existe jurisprudencia suficiente que

genere en la entidad perceptora de las subvenciones un derecho subjetivo por tanto yo concluiría

nuestra percepción acerca de lo legal o no legal de la forma de proceder del gobierno y en todo caso si estuviéramos hablando de un precepto legal

la haría no solamente a un departamento concreto sino a todos refiriéndose a todas las subvenciones no no hace concreta específicamente unas en cuanto a la vertiente política es creo el asunto que tenemos que tratar en este foro político

acostumbrados al pacto conocemos el valor de la palabra y tratamos de cuidar los compromisos que adquirimos y podemos discutir podríamos discutir

podríamos discutir sobre eso pero discutir sobre si hay o no un acuerdo mire nosotros hemos hablado con el departamento de hacienda obviamente pero es que no hace falta

es decir el uno de enero de este año se prorroga el presupuesto del dieciocho porque no había una ley presupuestaria que la sustituyese

tres medidas en una sola ley en vistas de que no iba a tener el beneplácito de las tres en su conjunto las presenta por separado y cada partido

de su ideología política por tanto de qué pacto estamos hablando señor barrio lo ha repetido usted cinco veces yo creo que tenemos que hacer honor a la verdad

ez dituzte eman por tanto yo le emplazaría

triquiñuelas parlamentarias y fueran a la negociación presupuestaria que se abrirá o que se ha abierto ya

estaremos veinte minutos más hablando de esto porque tendremos que interpelar al señor azpiazu desde luego porque

portavoces del gobierno nos ha sacado de las dudas y me decía usted que

le agradezco la clase de alta política que me ha dado aquí en estos cinco minutos

yo sabré qué política tendremos que hacer le agradezco los consejos pero yo sabré qué política tenemos que hacer en relación

la interpretación de las partidas nominativas de los presupuestos a usted no le gustan las partidas nominativas bueno no ha tenido la oportunidad todavía de negociar unos presupuestos parece que está ahora

pero no le aseguro mucha suerte en los cumplimientos con el gobierno vasco no se lo aseguro

no se lo aseguro y en ese sentido pues ahí estamos el señor arruabarrena me critica porque solo me refiero a cultura

no sé pónganse por favor de acuerdo porque en el tema este desde luego que les tengo que decir sí existe un acuerdo porque

es decir no he hablado el señor zupiria y tampoco ha hablado el señor arruabarrena en relación con los acuerdo

dos mil diecisiete dos mil dieciocho y la ley dos mil diecinueve de prórroga

y el resto de cuestiones relativas a la prórroga y que lo hemos acordado

que decir pero y además es que se quita el tema de encima diciéndome buh que no hay expediente administrativo pues que lo abra pero

no va a ir el club de baloncesto femenino a abrir el expediente

por favor señor arruabarrena creo que esto es una cuestión un poco más seria que como no hay expediente administrativo pues no se cumple la partida

el expediente administrativo lo tiene que abrir pues el director de deportes el señor zupiria o el señor

la posibilidad de hacerlo en relación con esas partidas presupuestarias hombre por favor eso

y que se cumpla la ley usted se lo despacha como triquiñuelas pues eso es falta de seriedad yo pensaba que me iban a dar alguna clave más como la señora corcuera no pues es que no se ha cumplido es decir ya no sabe que hemos negociado con el señor azpiazu vamos a ver

de hacienda del gobierno que usted apoya o sea que lo que haga el señor azpiazu en relación con

igual que a estos señores igual que a nosotros que nos sentíamos vinculados a ese acuerdo aquí de todas maneras con los acuerdos presupuestarios del gobierno es decir es que

qué pasa con los seres humanos con los seres vivos pues miren

crecen se reproducen y mueren no es el ciclo vital qué pasa con otra gran generación de vida las estrellas qué pasa con las estrellas que nacen crecen

esas explosiones épicas cósmicas las supernovas el polvo de estrellas que crea más estrellas que crea planetas satélites impresionante crea los neutrinos atravesando

en este momento pero qué pasa con los acuerdos del gobierno vasco que nacen